último trámite para la aprobación de este proyecto de presupuestos que saldrá con el voto favorable del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi yo

estos minutos de intervención para básicamente repetir las mismas cosas que he venido defendiendo en el último mes en el último mes y medio de tramitación parlamentaria explicaré las razones por las cuales upyd votará en contra de este proyecto de presupuestos explicaré también cuáles son las enmiendas parciales que hemos mantenido durante todo este tiempo y que pensamos que son necesarias para mejorar este proyecto de presupuestos

algunos pactos que ha habido entre distintos partidos políticos para incorporar a este proyecto de presupuestos algunas enmiendas en concreto aquellas enmiendas presentadas por el grupo socialista y aprobadas en comisión

nacionalista vasco quiero decir que no voy a decir creo nada nuevo en relación a lo que he dicho durante todas estas semanas y que seguimos pensando que este proyecto de presupuestos no es el proyecto de presupuestos que necesita la ciudadanía vasca

del partido nacionalista vasco pienso que debería existir una alternativa no solamente presupuestaria sino política al gobierno del partido nacionalista vasco

ideas y hacerlo con el mismo convencimiento que lo he hecho durante todo este tiempo antes de nada quería empezar diciendo que evidentemente

hay que reconocer que efectivamente gozamos de un bienestar claramente superior al de la mayoría de las comunidades autónomas españolas

suele exponer la representante del partido nacionalista vasco para atacar a los grupos que critican este proyecto de presupuestos por lo tanto quiero decirlo yo antes que nadie

reconocemos que no hay en españa nada comparable al sistema vasco de protección social que existe a día de hoy en euskadi no existe nada parecido a la renta de garantía de ingresos que disfrutamos en el país vasco no existe nada parecido a la prestación complementaria de vivienda que disfrutamos en euskadi y que efectivamente dedicamos cantidades de dinero

a la educación al gasto social que son superiores a las cantidades de dinero que dedican las restantes comunidades autónomas y por lo tanto esto hay que reconocerlo pero en todo caso quiero decir que este no es el debate ni la cuestión de hoy la propia señora gorospe

de upyd cuando reiteraba que estamos en una posición mejor que el resto de comunidades autónomas pero sin embargo pensamos que eso no es la cuestión no es el debate

que debatimos hoy no se trata por lo tanto de eso porque además la situación mejor en la que nos encontramos en relación al resto de comunidades autónomas no es consecuencia de lo que se ha venido haciendo durante los últimos meses no es consecuencia de este proyecto de presupuestos ni mucho menos

consecuencia de razones mucho más profundas labradas durante años y que responden evidentemente a un modelo productivo diferente al de la mayoría de las comunidades autónomas

o al modelo empresarial del que disponemos en euskadi

insisto que esta no es la cuestión y porque además y esto es a lo que

miles de ciudadanos que lo están pasando mal sigue habiendo en euskadi miles de ciudadanos que están en situación de crisis económica sigue habiendo miles de ciudadanos que están amenazados por posibles desahucios hay miles de ciudadanos que están sufriendo han sufrido durante los últimos tiempos y siguen sufriendo a día de hoy pobreza pobreza infantil pobreza energética hay miles de ciudadanos vascos que lo están pasando mal

mucha desigualdad que se ha incrementado por cierto durante los últimos años como consecuencia de la crisis económica y por lo tanto lo que habría que analizar

pensamos nosotros cuáles son los recursos disponibles de los que disponemos si podríamos tener más recursos disponibles para destinarlos a solucionar las necesidades reales de los ciudadanos y si efectivamente las partidas presupuestarias recogen las prioridades que necesitan los ciudadanos vascos y es ahí donde evidentemente se circunscribía

y donde se insertan también todas nuestras enmiendas parciales por lo tanto lo que creo que debemos hacer es analizar si podemos hacer

y mejorar euskadi y analizar si la distribución presupuestaria es decir las prioridades presupuestarias y políticas recogidas en este proyecto

y en relación a la primera cuestión pensamos que sí es decir que sí podríamos tener más recursos disponibles para dedicarlos realmente a lo que la ciudadanía necesita y en relación a la segunda cuestión

que las partidas presupuestarias podrían ser distintas y que las prioridades que recoge este proyecto de presupuestos podrían ser claramente diferentes para destinar

a lo importante en relación a lo primero en relación a qué es lo que podríamos hacer qué es lo que podríamos haber hecho durante los últimos años para disponer de más recursos disponibles y evidentemente ahí se insertan todas las que llevamos reclamando durante los últimos años

y que siguen sin llevarse a cabo me refiero a la reforma fiscal me refiero a la lucha contra el fraude fiscal me refiero a la necesidad de racionalizar el entramado institucional vasco

necesaria modernización y reducción también del sector público societario para destinar los recursos públicos a lo realmente importante es decir a procurar que haya

más gasto social más estado de bienestar y menos recursos que se destinen a cosas que son muchísimo menos importantes y en muchos casos innecesarias en lo que se refiere a la reforma fiscal esta reforma fiscal

de las diputaciones forales de las juntas generales de los territorios históricos fue pactada hace dos años por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi y supuso cierta mejora en relación al modelo tributario del que disponíamos sin embargo ya dijimos en aquel momento

había sido insuficiente y por lo tanto lo que seguimos reclamando a día de hoy es una fiscalidad que pueda ser más progresiva

más justa y que sea capaz de hacer disponer al gobierno de más recursos para destinarlo como digo al fortalecimiento

sin embargo esa reforma fiscal esos cambios fiscales siguen a día de hoy pendientes también en relación a la lucha contra el fraude fiscal hubo un pacto político entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

que sería la encargada de elaborar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal en nuestra opinión ahí también sigue habiendo un margen claro para todos los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal de esa forma de la misma forma que he dicho antes en relación a la reforma fiscal podríamos tener más recursos

a lo importante para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía y especialmente el bienestar de aquellos ciudadanos que siguen sufriendo a día de hoy como consecuencia

económica y de los recortes sociales de los recortes sociales impulsados durante los últimos tiempos tanto por el gobierno de españa como por el gobierno vasco

institucional formamos parte de una comunidad autónoma de apenas dos millónes de habitantes que dispone de cuatro parlamentos

de tres haciendas forales de tres políticas fiscales de un órgano de coordinación tributaria de doscientos cincuenta y uno municipios la mayoría minúsculos este entramado es un entramado que nosotros consideramos anacrónico

como saben todos ustedes este es un planteamiento que lleva defendiendo upyd desde el año dos mil nueve y que sigue pendiente un entramado institucional

que consume recursos públicos y cuando se consumen recursos públicos para sostener instituciones que son claramente superfluas lo que se está haciendo en realidad

que podrían dedicarse a lo realmente importante

a invertir en inversiones productivas y a facilitar la creación de empleo estable digno y de calidad sin embargo esta reforma

absolutamente nada en los últimos años llevamos años defendiendo la reforma de la ley de territorios históricos pero parece ser que no hay manera

una reforma de la ley de territorios históricos la última propuesta recientemente presentada por el grupo socialista es una iniciativa que queda corta en relación a lo que euskadi necesita y que además no solamente es que quede corta sino que incluso no va a poder salir adelante

por falta de tiempo y porque algunas diputaciones forales la han recurrido

que no hay voluntad política de reformar la ley de territorios históricos aunque por otro lado upyd piensa que ha pasado el tiempo ya de reformar la ley de territorios históricos y que lo que habría que hacer es derogarla porque evidentemente esta medida debería ir acompañada de otras como la propia reforma

las propias juntas generales de los territorios históricos y las propias diputaciones forales con lo cual evidentemente no tendría ningún sentido

de territorios históricos durante todo este tiempo nosotros hemos defendido esta idea de la reforma del entramado institucional vasco mil veces repetido por este servidor público y la verdad es que da la sensación de que no hay manera que esta idea pueda salir adelante sin embargo el mantenimiento de este entramado institucional vasco evidentemente condiciona este proyecto de presupuestos ha condicionado

de que condicionará todos los futuros por lo tanto

lo que hace es que no destinemos el dinero público a lo realmente importante y queda además una reforma pendiente que es la modernización del sector público societario algo de lo que hemos hablado

que durante la anterior legislatura de este asunto se habló mucho más que durante los tres años de esta legislatura otra reforma pendiente

la reducción el redimensionamiento del sector público societario decenas centenares de empresas públicas entes y fundaciones que siguen consumiendo recursos públicos convertidas prácticamente

para que un partido u otro o todos ellos coloquen ahí a su gente para que puedan seguir cobrando dinero público

y esta es otra de las reformas pendientes por lo tanto tenemos la reforma fiscal pendiente para tener una fiscalidad más justa y progresiva tenemos

tenemos el mantenimiento de este arcaico entramado institucional vasco que sigue consumiendo recursos públicos y tenemos un sector público

claramente sobredimensionado mientras estas reformas no se lleven a cabo evidentemente no podremos tener el mejor proyecto o los mejores presupuestos posibles que atiendan a las necesidades reales de la gente por lo tanto

no hay voluntad de llevar a cabo estas reformas si se hubieran llevado a cabo estas reformas el proyecto de presupuestos sería distinto y esta es evidentemente una de las razones para haber presentado en su momento nuestra correspondiente enmienda a la totalidad

de toda esta argumentación nosotros teniendo en cuenta esa realidad actual teniendo en cuenta esa fiscalidad

teniendo en cuenta que ustedes no quieren modificar el entramado institucional vasco y en ese sentido son todos ustedes o la mayoría de ustedes representantes profundamente conservadores teniendo en cuenta que se quiere mantener como está el sector público societario

a través de nuestras enmiendas parciales al menos corregir en lo que podamos la distribución de los recursos públicos es decir a dónde

nosotros presentamos cuatrocientos diecisiete enmiendas a la administración general dos a los organismos autónomos y setenta y tres a los entes y sociedades públicas es decir

por departamentos proponemos aumentos de noventa y cinco millónes en desarrollo económico y competitividad y cincuenta y cuatro millónes en empleo y políticas sociales

por la reactivación económica y la creación de empleo también

parciales demostrando por lo tanto que hay alternativa presupuestaria a este proyecto de presupuestos proponemos incrementos de noventa y cinco millónes de euros

millónes de euros en salud lo que muestra nuestra apuesta por el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales proponemos también aumentos de más de once millónes de euros para la cooperación al desarrollo seis coma tres millónes para justicia seis coma seis en seguridad

en medioambiente es decir que efectivamente había alternativa

si se observa cuáles son las enmiendas parciales que ha presentado upyd se demuestra claramente nuestra apuesta por el fortalecimiento del estado

provocar esos incrementos en partidas que nosotros consideramos esenciales hay que reducir de otras partidas porque habitualmente

me suelen recordar es que ustedes plantean una reducción de no sé cuántos millónes en la euskaldunización o una reducción de cuarenta millónes en eitb claro pero lo destinamos a otra cosa

más ayudas sociales más salud más inversiones productivas porque pensamos que eso es importante si ustedes hubieran llevado a cabo esas reformas pendientes

no haría falta reducir ni una sola de esas partidas pero

a dónde dedicamos nuestros recursos públicos y nosotros preferimos destinarlos a las ayudas de emergencia social al estado del bienestar a la salud y a la educación y a tantas otras cosas que creo que son mucho más importantes

de la ciudadanía más si tenemos en cuenta que atravesamos una crisis económica que ha hecho que muchísimos ciudadanos vascos hayan sufrido durante todo este tiempo muchísimo por lo tanto en fin estas son algunas de nuestras enmiendas parciales proponemos un incremento de casi tres millónes de euros para justicia gratuita

proponemos dentro de lo que sería desarrollo económico y competitividad como he dicho incrementos de

crear empleo estable digno y de calidad proponemos incremento de dieciocho millónes de euros para la educación infantil

consideramos que es un asunto evidentemente relevante consideramos

presentamos enmiendas que proponen su incremento en diez millónes de euros veinte millónes de euros en lo que se refiere a la enseñanza universitaria

más de cuatro millónes y medio de euros en lo que se refiere a innovación

más de tres millónes de euros en educación de personas adultas un incremento de más de cinco millónes para becas no universitarias

con discapacidad más de uno coma cinco millónes de euros para becas de aprendizaje de idiomas en el extranjero en fin uno millón de euros

casi un millón de euros más becas de colaboración en fin

dirección de patrimonio cultural siete millónes o investigación en la upv

proponemos también incrementos sustanciales en lo que se refiere a la salud pensamos que hay margen evidente para mejorar las partidas destinadas

la salud más de diez millónes de euros en lo que se refiere a material sanitario más de dieciocho millónes de euros en lo que se refiere a atención primaria dieciséis millónes de euros para centros hospitalarios cuatro millónes para centros psiquiátricos cuatro millónes más para transporte sanitario tres millónes más para investigación

etcétera que por lo tanto demuestra nuestra apuesta por el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales

del estado del bienestar proponemos también un incremento de ocho millónes de euros para las ayudas de emergencia social uno millón de euros más para teleasistencia

luchar contra la pobreza energética cinco millónes de euros más para la conciliación de la vida

y laboral más dinero para más vivienda pública en alquiler más dinero también para luchar contra la violencia machista y proponemos la supresión de determinados organismos que consideramos que son absolutamente superfluos y que no sirven para mejorar la vida de la gente con lo cual como digo se demuestra alternativa a este proyecto de presupuestos y creo que nuestras enmiendas parciales así lo demuestran el grupo socialista

a través de sus enmiendas y a través de su pacto político con el partido nacionalista vasco ha llevado a cabo digamos fraudulento de lo que debería ser cualquier tipo de negociación presupuestaria en respuesta al señor prieto tengo que decir que

a determinados ayuntamientos sino que se dedique únicamente a determinados ayuntamientos en concreto a ayuntamientos y a todos los ayuntamientos que tienen alcalde socialista y que este sea el último requisito a cumplir o el único la única condición el criterio

clientelismo esto se llama amiguismo y este es el tipo de enmienda que ha acordado el grupo socialista con el partido nacionalista vasco

ustedes señores socialistas digan que quieren reformar la ley de territorios históricos para garantizar la máxima igualdad posible en euskadi o que

de boquilla que los vascos debemos abonar impuestos semejantes y recibir prestaciones parecidas independientemente del lugar donde vivamos

de este modo tratando de destinar más recursos públicos a determinados ciudadanos por el simple hecho que su alcalde sea un alcalde socialista

y esto evidentemente hay que denunciarlo como lo hemos denunciado durante los últimos años se fomenta por lo tanto de esa forma el amiguismo y la desigualdad ciudadana

un puñado de votos es ciertamente lamentable en fin pero ese es el tipo de enmienda que ha pactado el grupo socialista con el partido nacionalista vasco más importante que ha pactado el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco en lugar de tener una visión de país o de comunidad autónoma

todos los ciudadanos vascos y especialmente a los ciudadanos que peor lo están pasando en lugar de incrementar más todo lo que tiene que ver el estado del bienestar las ayudas de emergencia social la lucha contra la pobreza energética el grupo socialista de la mano del partido nacionalista vasco lo que hace es destinar dinero público a determinados ciudadanos por el simple hecho de que vivan en determinados municipios y esto es profundamente injusto y profundamente

antes y recogen lo que nosotros pensamos que debe hacerse en euskadi en fin esto es básicamente lo que he venido diciendo durante las últimas semanas no me voy a alargar más estas son las razones por las cuales presentamos todas estas enmiendas parciales las razones por las cuales presentamos en su momento la correspondiente enmienda

y las razones por las cuales votaremos en contra de este proyecto de presupuestos había alternativa una alternativa mucho más social

había capacidad suficiente para destinar más dinero a educación

más a todo eso que interesa mucho más al conjunto de la ciudadanía sin embargo se ha mantenido gasto superfluo se ha mantenido

que se destine dinero público más de dos millónes y medio de euros de dinero público a mantener

que no necesitamos se destina más de cien millónes de euros a la euskaldunización y más de cien millónes de euros a una eitb que a día de hoy lo que básicamente es es un instrumento del partido nacionalista vasco para beneficiar

con todos estos mimbres es evidente que no podemos apoyar este proyecto de presupuestos con todos estos mimbres es evidente que votaremos en contra de este proyecto de presupuestos

continuista profundamente conservador que prefiere dejar todo básicamente como está

y que da la espalda a las necesidades reales

y votaremos en contra de este proyecto de presupuestos muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza

muchas gracias señora presidenta la verdad es que podíamos dar por defendida las enmiendas acabábamos antes y

esta es la conclusión del pacto pnv psoe en este trámite

en la que vimos las enmiendas nosotros evidentemente presentamos más de quinientos ochenta enmiendas a este presupuesto de las cuales

lo cual responde evidentemente al pacto que se suscribió

pero evidentemente es un pacto político no es presupuestario es excluyente es sectario por las partidas que hemos visto y al final es un intercambio de votos pnv psoe psoe pnv en otras instituciones

hoy aquí nos decía no ya la semana pasada sino hace algo más de quince días la representante del partido socialista

que a la ciudadanía le conviene contar con herramientas en favor del empleo que mejoren las cuantías para la sanidad y la educación públicas para la investigación y la innovación

y nosotros tenemos que decir que estábamos de acuerdo con eso que planteaban lo que pasa es que no hemos visto ese reflejo ni en el presupuesto que venía del gobierno ni en las enmiendas que ha planteado el partido socialista y evidentemente que se han aprobado todas por el partido nacionalista vasco

la portavoz socialista en fin que

en el trámite que quedaba para intentar convencer al gobierno de que

conseguirlo los demás y digo que tiene su gracia que el partido socialista nos dijera eso en el debate de totalidad cuando su pacto y su acuerdo consistía precisamente en que no se aceptara ninguna enmienda de ningún grupo con lo cual

simplemente quiero decirles que en fin que queda muy bien sobre el papel pero en fin como todos somos ya mayorcitos aquí y todos sabemos y hemos visto en qué ha consistido el pacto

de cómo en fin los socialistas han conseguido grandes cosas

y los demás no sabemos no aquí hay un pacto sectario

que consiste en eso en que no se apruebe ni se negocie absolutamente ninguna enmienda y además para eso ya se encargaron ustedes de vaciar la partida del crédito global porque entre sus enmiendas

a la baja ninguna ni una sola partida a la baja de todo el presupuesto presentado por el gobierno vasco por el partido nacionalista vasco

ni una y todas eran contra el crédito global por lo tanto en fin lecciones yo creo que

y el partido nacionalista vasco cuando nosotros decíamos que este presupuesto consolidaba los recortes

que llevamos años el partido nacionalista vasco nos hablaba del artículo ciento treinta y tres de la constitución española y es que el artículo ciento treinta y tres de la constitución española

de estabilidad y yo como parto de la base de que el partido nacionalista vasco está de acuerdo con europa está de acuerdo con el euro está de acuerdo con los principios

en fin ustedes y nosotros en su momento llegamos a acuerdos en esa materia pues no entiendo porqué la excusa siempre es otra no oiga vamos a ver cada gobierno para cumplir los objetivos de déficit ajusta el presupuesto donde le interesa

de ajustar el presupuesto donde le interesa hay unos gobiernos que recortaron en su día el cinco por ciento del sueldo de los funcionarios es una decisión de los gobiernos ni europa ni el artículo ciento treinta y tres de la constitución dicen que hay que recortar el sueldo de los funcionarios

entonces como excusa de es que la culpa aquí de las cosas siempre la tienen otros

y no buscarse enemigos fuera el artículo ciento treinta y tres lo que dice es que las deudas se pagan pero eso ya lo sabíamos y cuando alguien ha ido por ahí diciendo que no va a pagar la deuda

usted verá eso es lo que dice el artículo ciento treinta y tres que las deudas se pagan

se puso ahí a iniciativa de sus socios para garantizar más y mejor a los acreedores que iban a poder cobrar sí sí que iban a poder cobrar

y el partido nacionalista vasco nos decía que es gracias al pacto que hace tres años firmaron con los socialistas y gracias a esas yo me acuerdo perfectamente en qué consistía ese pacto y yo me acuerdo perfectamente cómo se iba a financiar

no se sabe sí se sabe sí iban a aparecer por la reforma fiscal pero sobre todo por la lucha contra el fraude fiscal y más de tres planes trajo este gobierno que se iban a financiar con la mayor recaudación de la lucha contra el fraude fiscal y al final la lucha contra el fraude fiscal pues da de sí lo que da de sí que era lo que ya daba de sí verdad porque ustedes y nosotros y todos sabíamos que en fin no es ninguna novedad

y que por lo tanto esos miles de millónes de euros que iban a venir pues como sabíamos todos no han venido

respecto al del año pasado y simplemente porque la economía ha crecido y simplemente porque básicamente

y dónde van esos trescientos millónes que es lo que nosotros decíamos pues van a lo que van a pagar la deuda como no podía ser de otra forma

el otro día pues que no veíamos por ningún sitio ninguna medida nueva novedosa o ningún incremento de las partidas que incentivaran la creación de empleo

y la portavoz del partido nacionalista vasco nos decía no pero es que ustedes no se han fijado

claro pero por qué no estaba esa partida en el fondo de innovación si era para el fondo de innovación por qué no estaba incluida allí porque luego es de esas que se como decía

que esas que se inejecutan no esa era la palabra que utilizaba claro

y nosotros lo que le decíamos en cualquier caso es que nosotros con nuestras enmiendas incrementábamos en otros diez millónes

por qué y así y todo le decíamos y ni siquiera estamos llegando a las cuantías que teníamos hace cuatro años y entonces el partido decía que es que en otros sitios están peor oiga pues peor para ellos

nosotros nos fijamos en los vascos y lo que nos interesa para los vascos y lo que queremos para los vascos y nos comparamos con nosotros mismos como le dije el otro día y por eso nosotros planteábamos el incremento de esa partida que estamos todos de acuerdo porque yo parto de la base de que estamos todos de acuerdo yo le oigo al partido socialista y

hablan de la prioridad y oiga luego resulta que aquí

y esto pues parece que va en contra de lo que todos pensamos que es bueno para los vascos y para el empleo futuro de los vascos

el presupuesto sigue consolidando organismos y sociedades que nosotros ya lo dijimos y hace años que estamos planteando

y nosotros sí hemos hecho enmiendas para evitar ese recorte social que se produce en estos presupuestos por qué

pnv partido socialista lo que hace es evitar recortes sociales no los consolida los consolida

como tenemos menos dinero pues vamos a recortar aquí

no le obliga a recortar nadie nadie le obliga al gobierno vasco

el gobierno vasco el partido nacionalista vasco con los votos del partido socialista decide que no se devuelve la paga extra nadie le obliga al gobierno vasco a que las aportaciones que se hacía a los fondos de los funcionarios no se hagan es más yo me acuerdo perfectamente como el partido nacionalista vasco en madrid presentó la enmienda para que se pudiera hacer

efectivamente que los gobiernos puedan hacer las aportaciones a los fondos de los funcionarios pero luego llegamos aquí

y no las hace y nos dice la culpa es del ciento treinta y uno de la constitución no es una decisión del pnv y del partido socialista de no hacerlo recortar ahí y eso hay que decirlo y explicarlo como es una decisión del partido nacionalista vasco y del partido socialista recortar el siete por ciento de la rgi

o recortar el siete por ciento de las ayudas a la conciliación familiar y laboral pero eso es una decisión política que viene en este presupuesto

y por lo tanto nosotros como no estamos de acuerdo en eso yo supongo que nadie estaba de acuerdo en eso o a nadie le hubiera gustado hacer eso pero el hecho cierto es que se hace

a la cooperación al desarrollo pero quizás lo que sea más lamentable de todo esto

el otro día es que en este parlamento nos pasamos mes tras mes viendo iniciativas de supuestos grupos de la oposición que nos dicen que hay que destinar más dinero para las ayudas de emergencia social que hay que destinar más dinero

resulta que eso no lo vemos ni en el presupuesto del gobierno ni en las enmiendas que se aprueban del partido socialista

cuando el mes que viene veamos otra vez las mismas propuestas de los mismos diciendo

se niegan hacerlo y en este caso no es por no convencer al gobierno en este caso es porque el partido socialista sus prioridades son otras y son otras tan lamentables como algunas de las que en su momento ya hablamos es decir oiga destinar mil euros a una coral o cinco mil a un club de fútbol otros cinco mil a un club de hockey verdad

eso sí todos del mismo pueblo o a un club de bicicleta

esta es la prioridad del partido socialista en estos presupuestos y no nos vengan diciendo que las ayudas de emergencia social porque la cantidad

para nada por lo tanto yo no me voy a extender mucho más porque no tiene mucho sentido

a convencer a nadie y aunque estuvieran convencidos como el pacto es no aprobar absolutamente nada pues no van a aprobar nada pero nosotros sí queremos

un par de cositas más estamos hartos y llevamos ya muchos años no este gobierno este gobierno y todos los gobiernos anteriores de que la mitad del texto articulado la primera mitad del texto articulado se dedique a modificar la ley general presupuestaria

digamos manipular la ejecución del presupuesto y

de que si el partido nacionalista vasco y el partido socialista están tan de acuerdo en eso

claro pero no tengamos una ley que dice que hay que tener mucho rigor en el gasto y luego llega el presupuesto y se modifica puntualmente cada año y llevamos más de veinte años modificando puntualmente las mismas cosas

eso por un lado y evidentemente nosotros presentamos como enmiendas y como texto alternativo oiga que sí que se devuelva la extra a los funcionarios oiga ya que

el recorte del siete por ciento a las aes a las ayudas a la conciliación y a las familias sin hijos y ya que todos estamos de acuerdo

si es una preocupación que tanto preocupa en este parlamento a todos los grupos

hoy es el momento hoy es el trámite para hacerlo no es en pnl a lo largo de todo el año

aquí y ahora hoy aquí y ahora y por lo tanto como ya dijimos el otro día

porque el gobierno no toma ninguna medida para tener más margen como ya dijimos no aporta nada nuevo ni siquiera euros para el fomento del empleo consolida los recortes sociales

aquí se crea empleo cuando en españa se crece económicamente y se crea empleo y cuando en españa se decrece

y se incrementa el paro y por lo tanto un gobierno autonómico

con mucho margen de maniobra más margen demaniobra que ningún gobierno autonómico ni federal ni confederal del mundo mundial porque este es el que más margen de maniobra tiene en el ingreso y en el gasto

y nosotros seguimos sin verlo y como encima

lo que hacen es todavía empeorar el presupuesto que se nos ha presentado porque veinte millónes que estaban en el crédito global para la inversión se dedican a gasto corriente y cuando se dedican a gasto corriente me estoy refiriendo a gasto corriente como el que he citado como el de los bolos la petanca y estas cosas de determinado pueblo

y en ningún otro más pues es evidente que vamos a votar en contra del presupuesto eskerrik asko damborenea jauna

que vuelven a dar la espalda a las necesidades de la sociedad vasca unos presupuestos que siguen la senda errónea marcada por el gobierno vasco al inicio de esta legislatura una legislatura que va camino de terminar según datos del propio gobierno con treinta y uno mil personas más en riesgo de pobreza grave

en riesgo de pobreza relativa en total en álava bizkaia y gipuzkoa

que viven en riesgo de pobreza pero para ellas estos presupuestos lamentablemente no van a tener ninguna solución real

que ponen de manifiesto el fracaso de las políticas de empleo de este gobierno vasco y lo que es aún peor cuando un sindicato

para garantizar condiciones laborales dignas en las contrataciones que hace el propio gobierno vasco

ustedes señores y señoras del pnv y del pse dicen que no que no están de acuerdo que prefieren seguir como hasta ahora

euros la hora trabajadores y trabajadoras explotadas

sigan acumulando beneficios señores y señoras del pnv y del pse

y ustedes responden con la reforma laboral ustedes se unen al partido popular eta hori guztia ez da gertatzen gauzak berez horrela datozelako

caduco que se niegan a modificar la política fiscal a la espera de unos resultados que no llegan señorías

en la sociedad sí que hay un deseo de dar pasos para que la fiscalidad sea justa de verdad

para unos servicios públicos de calidad el sociómetro vasco muestra cómo el sesenta y dos por ciento de la población

para tener mejores servicios y prestaciones y el deustobarómetro completa esta fotografía

con porcentajes que deberían sonrojar a confebask y a ustedes también

siguen empeñados en mantener un modelo fiscal que solo favorece a las grandes empresas que solo favorece a las grandes fortunas

no sirve para recaudar el dinero que hace falta el dinero que hace falta que necesitamos para garantizar empleo que necesitamos para garantizar una atención social educativa y sanitaria de calidad al conjunto de la ciudadanía

son las políticas de la austeridad las que están en la base de estos presupuestos recetas viejas recetas repetitivas que ya se han demostrado ineficaces

la crisis y sus perniciosos efectos sobre las personas

el eje de estos presupuestos no son las personas y su bienestar no por mucho que insistan estos presupuestos como el propio gobierno se limitan a cumplir el expediente sin más estos presupuestos están cuadrados estos presupuestos pagan la deuda estos presupuestos cumplen con los límites

sin acuerdos y no es que lo diga yo no es que lo diga euskal herria bildu lo dice el propio ministerio de hacienda estatal en su informe

el consejo de ministros del pasado diez de julio fijó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos al trienio dos mil dieciséis dos mil dieciocho

a fecha de este informe considerando la especialidad del régimen foral en materia de estabilidad presupuestaria está pendiente de firma el acuerdo previo entre la comunidad

dos mil dieciséis dos mil dieciocho repito pendiente de firma el acuerdo previo

autónoma y la administración general del estado pero por lo visto este gobierno va a llevar a acordar

aquel diez de julio pasado y conseguirán acuerdo por supuesto porque así es fácil acordar haciendo siempre lo que dice el de enfrente es muy fácil acordar estatuko gobernuarekin

aitor esteban partido nacionalista vasco es verdad que hay que hacer un control del déficit

porque en vez de tres años se haga en ocho o en diez la austeridad no ha funcionado es una receta del pasado pedro sánchez partido socialista no va a ser posible cumplir con el objetivo del déficit de diez mil millónes de euros le voy a decir a bruselas que con esta herencia

es imposible cumplir con el objetivo del déficit para cumplir con el déficit sin subir impuestos será necesario recortar el estado

hemos agotado las vías para lograr unos presupuestos al servicio de las personas para garantizar los derechos sociales para todos y todas

no se vuelvan a terminar mediado el año y no haya nadie más que escuche el vuelva mañana para eliminar de una vez por todas la reducción del siete por ciento de las ayudas sociales que viene aplicando el gobierno desde el año dos mil doce que no es más

para recortar derechos sociales para desarrollar unas políticas de conciliación reales en pos de la igualdad y sin que el presupuesto se acabe

para reforzar el sistema sanitario acabar con el repago y mejorar las listas de espera para realizar una apuesta clara por una educación

honen akordioak dira legebiltzar honek jaurlaritzari emandako aginduak dira porque para euskal herria bildu lo que acordamos en este parlamento

son compromisos adquiridos con la ciudadanía y como tales como compromisos los traemos al debate presupuestario y por eso mismo nos dirigimos en su momento al pse como firmante de esos acuerdos

respondieran a lo acordado respondieran a la ciudadanía pero si algo que ha quedado claro meridianamente claro es que el pse se ha enmendado a sí mismo

sobre la conciliación sobre la mejora de las condiciones de los empleados públicos sobre la sanidad la vivienda o el desarrollo económico de este país

por el maquillaje superficial en todos estos temas y por repartir cual olentzero unos cuantos millónes entre ayuntamientos que gobierna fundaciones afines y asociaciones varias

no ha habido dinero suficiente para cubrir todas las necesidades y los ayuntamientos una vez más han tenido que buscarse la vida para atender a la ciudadanía y no es que lo diga euskal herria bildu lo dice eudel lo dice santano lo dice

y cito el gobierno vasco debe asumir el cien por ciento del gasto y añade

corta todos los años pues más de lo mismo para el dos mil dieciséis señor santano porque con estos presupuestos tampoco va a llegar a cubrir todas las necesidades y lo mismo lamentablemente ocurre con las ayudas a la conciliación el despropósito del despropósito

omen ematen quienes estamos aquí en este parlamento estamos para garantizar condiciones de vida dignas a toda la ciudadanía de araba y gipuzkoa y los presupuestos los debemos utilizar para eso

por eso en euskal herria bildu pensamos que la pregunta a realizar es qué necesita la sociedad vasca para luego actuar en consecuencia

que no sean nuestras propias limitaciones como sociedad pero ustedes en cambio antes que nada se preguntan qué nos dejan hacer en madrid incluso cuando saben de antemano que la respuesta está a años luz de lo que necesita este país

por eso se niegan ustedes por ejemplo a tramitar una ilp que propone subir las pensiones

o como estamos hoy aquí hablando aplican en los presupuestos unos criterios de austeridad que impiden un desarrollo social y económico

parafraseando al lehendakari ibarretxe diré que menudo autogobierno que no nos deja ni decidir qué pensiones pagar a nuestros pensionistas guk horren aurrean diogu

tanto presumir de que el pse había acabado con el fracking para que luego venga la señora tapia

pero es que ha sido el propio gobierno el que ha terminado dejando su juego al descubierto

pero escuchen cómo ha respondido la señora tapia a las preguntas de mi compañero

pregunta clara y directa la eliminación de los párrafos de la memoria del presupuesto supone que la empresa sesa renuncie a los permisos de investigación angostomenos uno y enara

no menos clara y concreta no es de agradecer la claridad de la señora tapia porque más claro el agua señores socialistas ni el pnv ni el gobierno vasco renuncian al fracking ni renuncian a saltarse la ley que ha aprobado este parlamento

lo dan por bueno y hoy lo van a apoyar con sus votos se lo repito la amenaza del fracking

no se llama enara la amenaza del fracking se llama sesa mientras se mantenga esta sociedad pública se mantiene el fracking es para unos presupuestos que no sirven para satisfacer las necesidades de este país eta hori

ez bada esaten izan duzu que existe alguna alternativa política al gobierno vasco aipatu duzu baina hori herritarren esku dago

eta esan duzu que el estar mejor es un argumento que el partido nacionalista vasco utiliza

para atacar a la oposición me gustaría decirle que no es en absoluto un argumento cuya voluntad sea atacar a la oposición nuestra voluntad es defender y argumentar

estratégicas que se están apoyando con ese presupuesto nosotros lo hacemos con el ánimo de defender en ningún caso de atacar el ataque es cosa suya lo nuestro es la defensa de aquello que consideramos que es mejor para este país

no consideramos que sea caer en la autocomplacencia en este argumento ha coincidido usted con la representante de eh bildu que

del entorno y hacer un análisis comparativo con otros países de europa en aquellos ámbitos de intervención del gobierno vasco sea caer en la autocomplacencia o pueda pensarse que esa es la voluntad es un ejercicio que en muchos sitios se hace en muchas empresas se hace y también en el ámbito público debe hacerse para compararse con todo el entorno

está mejor cómo estamos posicionados y de esa forma poder

se está haciendo un proyecto y una apuesta de mejora continua de nuestra intervención ahora los indicadores son objetivos utilizamos indicadores cuantitativos para ese análisis y de la lectura de esos indicadores cuantitativos la conclusión que se extrae como usted también

es que efectivamente estamos bien posicionados pero en absoluto la voluntad es caer en la autocomplacencia jarraitu duzu esanez euskadin

señor maneiro de este gobierno vasco son las personas y entre las personas aquellas que mayores dificultades y aquellas que en peor situación están

que el proyecto presentado sea claramente social destinando un setenta y cinco por ciento a gasto social no tenga ninguna duda

baina ez dago gehiago hay para todo para todas las políticas

abordarse sanidad educación política social reactivación económica generación de empleo inversiones hay para todo pero no hay para más y por tanto las posibilidades

no existen hemos mejorado se ha presentado un buen proyecto un buen proyecto con clara vocación social y se ha mejorado con el acuerdo adoptado con el partido socialista en determinados aspectos se ha mejorado por ejemplo en aspectos como que a la ayuda de la conciliación familiar se destinarán

a la ampliación para la partida del contrato relevo uno millón más para euskaltzaindia cincuenta mil euros más para un programa de empleo y formación de parados

para la universidad del país vasco para la universidad de mondragón para un incremento de becas de formación de investigadores para proyectos plurilingües

uno millón para el tratamiento de la hepatitis dos millónes

para planes locales de empleo uno millón más para tecnología en elkartek

para educación en gestión económica de los centros públicos

son por ponerle algunos ejemplos también eta dirua mugatua da el dinero es limitado existen unas restricciones presupuestarias como usted bien bien sabe

ha sido el marco de acuerdo que hemos tenido

y un acuerdo sí hay un pacto plural de dos formaciones políticas que representan a una amplia mayoría social de este país

se refería usted a que continuamente el partido nacionalista vasco y nosotros nos referimos al artículo ciento treinta y cinco de la constitución

el gobierno vasco ni nosotros como grupo parlamentario ni el partido nacionalista vasco ni el gobierno vasco culpa a nadie asume la responsabilidad de la tarea que le corresponde

lo que sí hace es exponer cuál es el marco jurídico en el que nos desenvolvemos en materia presupuestaria y cuáles son las limitaciones que tenemos para poder abordar y tomar unas decisiones u otras y desde luego en materia presupuestaria hay dos

han sido aprobadas por el partido popular el artículo ciento treinta y cinco de la constitución que consagra la necesidad de cumplir el objetivo del déficit y priorizar el pago de la deuda y dos la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

es exponer cuál es el marco jurídico que está vigente en materia presupuestaria y nosotros lo cumplimos en absoluto es una excusa una excusa sería todo aquello que fuera soslayable y esto no es soslayable se ha referido

y preguntaba por qué estaba en la sección noventa y nueve decía hay

me parece que es una cantidad considerable y que el esfuerzo del gobierno vasco es considerable

porque es transversal y porque afecta a distintos departamentos como a educación como a desarrollo económico y se considera que

se ha referido también a la paga extra y los argumentos se los hemos dado pero es importante se los hemos dado en otros debates hoy va a ser el debate de repetir argumentos porque

pero es que es importante destacar que de ciento trece millónes este gobierno va a destinar sesenta millónes a retribuciones a mejorar

de los empleados públicos y que además tiene el compromiso de pagar el resto de la paga extra pendiente del dos mil doce

su estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera sesenta millónes de ciento trece millónes para retribuciones salariales cooperación cerca de un ocho por ciento de incremento hiru milioi berrehun mila

doscientos setenta y cinco millónes un ocho por ciento de incremento de verdad señor damborenea usted tiene que defender la posición política de su grupo parlamentario le corresponde hacer ese ejercicio pero cómo me gustaría saber lo que en su fuero interno usted piensa al respecto eh bildurekin

esan duzu que no hay acuerdo para cumplir el déficit

el único acuerdo vigente real suscrito es el que con esa fecha se suscribió entre la comunidad autónoma del país vasco y el estado

y en relación con el ejercicio dos mil dieciséis no solo el objetivo de déficit quedó fijado en cero coma tres

el objetivo del déficit para el dos mil diecisiete que quedó fijado en un cero coma uno por ciento decía

diga hayamos dicho en campaña que en lugar de tres años puede

de consolidación fiscal y en lugar de tres años sea de seis años pues efectivamente porque pensamos eso nosotros vamos a respetar lo que está

que debería ser más flexible que las comunidades autónomas deberíamos tener más capacidad de adaptar el objetivo del déficit y la deuda

a nuestra situación real porque evidentemente no es comparable

edo castilla la mancha murcia katalunia

la responsabilidad financiera y presupuestaria exigen continuar la senda marcada en el objetivo de mantener las cuentas públicas bajo control

refiriéndose a lo que hemos hecho en gipuzkoa bai ezta

en esta vida uno no puede es responsable de todas sus acciones

lo que no se puede pensar es que ustedes van a escribir esto en gipuzkoa

que no apelan a la obligación que españa y europa nos imponen no

exigen continuar la senda marcada con el objetivo de mantener las cuentas públicas bajo control y qué dicen de los créditos ampliables qué decían

piensan que todas las ayudas deben ser créditos ampliables porque el dinero y la caja pública

la situación de crisis lleva inexorablemente consigo

difícilmente calculable en el momento de presentación de los presupuestos

efectivamente la situación de crisis lleva inexorablemente consigo una progresión de gasto social difícilmente calculable en el momento de presentación de presupuestos como al gobierno vasco le resulta difícil

algunos aspectos como gastos ampliables como nosotros estamos incorporando

fueron ustedes la diputación de gipuzkoa la primera que aprobó una

para disciplinar a todos los ayuntamientos del territorio histórico de gipuzkoa en el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera firmes

y apelando a la responsabilidad financiera y presupuestaria hori da egia

horrela egingo dugu se sigue la senda errónea

llantos de plañidera me ha recordado una frase que el consejero darpón

dijo en la comisión de hacienda y presupuestos cuando él defendía el presupuesto de su departamento

no nos toca llorar a mí el lehendakari no me ha llamado para llorar a mí el lehendakari

y si ha llorado habrá llorado en su casa porque la situación en la que se comprometieron con este país era

y todos y todas han tenido claro que no les toca llorar les toca pelear

y para eso tenemos los recursos que tenemos y con valentía han seguido trabajando y con compromiso y con responsabilidad

no me hable de llantos de porque

sinceramente le digo nunca he oído llorar a un consejero o una consejera solo les he oído luchar y palabras de fuerza nik

talde guztiei pido su confianza nos decía el lehendakari

para afianzar la estabilidad de nuestro país para crear empleo de calidad para seguir creciendo y afrontar con mayores garantías el futuro de este país

sí gracias presidenta señora gorospe siempre hay alternativa a un gobierno se trata de

y trasladar credibilidad suficiente para explicar a la ciudadanía y al parlamento en este caso que efectivamente la alternativa que se propone es razonable y se puede llevar a cabo

que se puede llevar a cabo esa alternativa si se observan cuáles son las enmiendas parciales que nosotros hemos presentado no me refiero a que haya una alternativa política en este parlamento a su gobierno que tiene el apoyo del partido nacionalista vasco efectivamente esa

tienen ustedes la mayoría necesaria para aprobar este proyecto de presupuestos pero yo no hablaba tanto de partidos sino de ideas y lo que he querido demostrar con nuestra enmienda a la totalidad y en este caso con las enmiendas parciales es que efectivamente

distintos que atendieran realmente a las necesidades de los ciudadanos reconociendo como he hecho en primer lugar que efectivamente esta comunidad autónoma está mejor en general que el resto de comunidades autónomas españolas al fin y al cabo ya sabemos cual es la situación general del país y

sus ciudadanos compararnos con el entorno está bien y seguramente sea necesario incluso indispensable pero yo le pido un esfuerzo para que se compare en fin con aquellas regiones que están mejor euskadi es decir que no se compare con aquellas comunidades autónomas que están mucho peor sino que se compare con otras regiones europeas incluso que están

le pido que no olvide cual es la situación económica que siguen sufriendo muchos ciudadanos vascos seguimos teniendo un catorce por ciento de desempleo que es una cifra extraordinariamente elevada si nos comparamos con otros países europeos y que vivimos en una región donde

por lo tanto en fin no traslademos la idea de que todo va bien porque esto efectivamente no es así ciento cincuenta mil desempleados miles de personas que han sufrido mucho todos estos años

personas que han sufrido la pobreza la pobreza energética miles de personas que están en paro o que están en una situación de digamos empleo precario temporal y mal pagado y ciertamente es posible que estas personas a diferencia de los consejeros del gobierno vasco sí que lloren

y por lo tanto hagamos todo lo posible para atender a esas personas y creo que yo humildemente

que se podrían haber configurado unos presupuestos distintos y que haciendo las cosas de distinta manera se podría haber dedicado más dinero público para fortalecer el estado de bienestar más dinero para educación para sanidad para gasto social para ayudas de emergencia social

para becas para inglés para mejorar los centros educativos para mejorar centros hospitalarios y educativos para inversiones productivas para

para prestar mejores servicios públicos para incrementar lo que se destina a la cultura para mejorar el empleo

el medio ambiente para luchar con más recursos públicos también y más voluntad contra la violencia machista para luchar contra la pobreza para luchar contra la desigualdad para

en alquiler para más ciudadanos y también más dinero para cooperación al desarrollo las cosas que recogen nuestras enmiendas parciales no hemos presentado ninguna rareza en el sentido de en fin suprimir

al tren de alta velocidad cosa imposible sino que lo que hemos hecho es vamos a destinar el dinero público a lo que nosotros consideramos que es más importante

hemos reducido partidas que se destinaban inicialmente a la euskaldunización o la e i te be porque consideramos que eso es menos importante menos prioritario

argumento falta de reformas modernizadoras más de lo mismo

de prioridades este sería el resumen si se hubieran impulsado las reformas necesarias tendríamos más recursos si hiciéramos cosas distintas a las cosas que se han hecho es posible que nos modernizáramos y pudiéramos atender

las prioridades son las prioridades de este gobierno son las prioridades de un partido nacionalista vasco son las prioridades que tiene un partido que además recibe el apoyo del partido socialista

que había una alternativa para configurar unos presupuestos más sociales más sensibles y que pudieran también facilitar la creación

las razones que he explicado durante estas semanas para votar en contra de este proyecto de presupuestos se consolidan los recortes sociales impulsados durante los últimos ejercicios

a actuaciones innecesarias o no prioritarias antes le decía que había que fijarse en las regiones o países de nuestro entorno

en mejor situación en mejor situación también sería un buen ejercicio comparar la evolución de determinadas partidas

analizar todo eso efectivamente qué es lo que se ha destinado a educación qué es lo que se ha destinado a sanidad cuánto se dedicaba hace algunos años cuánto se destina ahora si lo que se presupuesta en lo que se refiere a las ayudas de emergencia social va a ser suficiente o no si efectivamente ha habido un recorte o no ha habido un recorte del siete por ciento

sí lo ha habido si efectivamente no se alcanzan los presupuestos mínimos en lo que se refiere a la cooperación al desarrollo hace algunos años se alcanzaban cuantías muy superiores etcétera y si observamos todo eso efectivamente

concluimos que hay muchas cosas que se podían hacer de modo distinto en fin ya digo se mantienen las delegaciones vascas en el exterior

en francia o en navarra no se hace el esfuerzo suficiente

más becas innovación competitividad emprendimiento no se presupuesta lo suficiente en ayudas de emergencia social

son muchos datos que yo he dado durante todas estas semanas que confirman que efectivamente lo que nosotros hemos dicho pues tiene todo el sentido

observamos que en educación se presupuestan más de doscientos millónes de euros menos que entonces si comparamos este proyecto de presupuestos con el proyecto de presupuestos de dos mil nueve

se destinan más de ochenta millónes de euros menos que entonces es decir efectivamente ha habido recortes o se han aplicado recortes que están hoy día consolidados se sigue destinando ciento veinte millónes de euros a e i te be del partido nacionalista vasco se sigue destinando más de cien millónes de euros a la euskaldunización

otros asuntos prioritarios se dejan de lado en fin estas son nuestras razones estas son nuestras razones

enmienda a la totalidad para haber presentado nuestras enmiendas parciales y hoy para votar en contra de estos presupuestos ya digo

insensibles continuistas y profundamente conservadores porque de la mano del partido socialista de euskadi lo que básicamente hacen es dejar todo como está y hay muchos asuntos que resolver euskadi tiene muchos problemas

dice algo digamos que sobra que primero hay que devolver lo que no es tuyo que es cuando te prestan dinero pues hay que sobre todo si quieres que te sigan volviendo a prestar porque es el interés propio pero bueno yo creo que no

me parece que no tiene mucho estímulo seguir hablando de este tema

este es un pacto presupuestario que yo he dicho que es un pacto presupuestario no yo no he dicho que es un pacto presupuestario he dicho que no es un pacto presupuestario he dicho que es un pacto político

el crédito global pasarlo directamente a las enmiendas sectarias sí sectarias señora gorospe sectarias a las enmiendas sectarias

un pacto presupuestario si no que es un pacto político evidentemente que era excluyente porque excluía a todos los demás grupos de poder negociar nada

y es vergonzante y es vergonzante porque los que lo suscriben los que lo van a aprobar ni lo defendieron hace quince días ni lo defienden hoy

porque del da vergüenza no han salido aquí a defenderlo vergonzante y usted me dice que es el mejor presupuesto posible para el pnv y yo

lo que pasa es que como yo no soydel pnv pues para mí no solo

y usted me preguntaba que le gustaría saber qué pienso yo en mi fuero interno pues estoy dispuesto a descubrirle mi fuero

que no me gusta que se gasten mis impuestos en francia ni en navarra que se gasten con sus impuestos y que se financien con lo suyo

no me gusta con mis impuestos y eso está en mi fuero interno me parece excesivo muy excesivo súper excesivo

me parece excesivo súper excesivo que con mis impuestos de mi fuero interno y de mi fuero externo nos gastemos más de cien millónes de euros en el euskera y que cada año se siga incrementando cuando lo lógico es que cada año

algo se ha hecho pero como responde a la excusa del euskera para financiar otras cosas que también es

como no me gusta que parte de mis impuestos se destinen a

embajador una secretaria y un local y que no nos sirven para nada no me gusta

en organismos se lo hemos dicho como el ika o ihobe

no me gusta el dineral que nos gastamos en publicidad este gobierno interno externo y mediopensionista ahí tengo el fuero ahí me molesta más

hombre y menos me gusta todavía que mis impuestos sirvan para financiar fundaciones del partido nacionalista vasco o del partido socialista

en cualquier caso reconozco que para ustedes es el mejor presupuesto

creo que cambiaron un párrafo sobre el fracking en una exposición de motivos de un capítulo de una página

fuera algo que tenga que ver en este tema en cualquier caso diré que somos el único grupo que nosotros sí hemos planteado en nuestras enmiendas en el proyecto de ley en el texto articulado que es donde corresponde y donde toca que los recortes

que el recorte de la paga extra no se produzca o que las ayudas de emergencia social tengan carácter digamos global ampliable

bueno estamos en las fechas que estamos hace quince días el lehendakari cuando presentó el presupuesto nos decía que el año que viene puede ser

ahora tengo más dudas de que vaya a ser un buen año pero en cualquier caso

un próspero año nuevo los que crean en el olentzero

y por lo tanto esperaremos con fervor la llegada y que llegue también a todas sus casas y por lo tanto el año que viene podamos disfrutarlos todos

gatzagaetxebarria que estoy seguro que el año que viene va a ser mucho mejor para él y para todos muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

para usted son los mejores presupuestos es obvio que para usted son los mejores presupuestos no les han tocado una coma y con treinta y cinco millónes de nada repartiendo alpiste algunos parece que han solucionado el futuro de este país pero han sido para repartir alpiste

a ayuntamientos gobernados por el partido socialista y no sumamos las fundaciones afines

vergüenza en unos presupuestos de una comunidad autónoma partidas de mil euros

vergüenza pero vergüenza ustedes sabrán qué tipo de pagos tienen que hacer o porque admiten ese tipo de enmiendas pero que esas enmiendas como usted ha dicho ha empezado a decir son enmiendas que han mejorado las políticas sociales y han ido en adelante mire aceras y rotondas dos millónes de euros

actuaciones en espacios urbanos en un municipio gobernado por el partidos socialista que no voy a nombrar un millón novecientos mil euros programa de parados mayores de cuarenta y cinco año

mas campo de futbol en otro municipio gobernado por el partido socialista cuatrocientos mil euros ayuda a cuidados de hijos e hijas menores de tres años

yo no necesito mucho más si estas enmiendas y este presupuesto

necesidades de la sociedad pues será que necesitamos campos de futbol aceras rotondas que dicho sea de paso

a este parlamento aprobar son de otras instituciones

con las ayudas sociales con la educación y con la sanidad de este país y ustedes hacen dejación que la relajación de la senda del déficit es lo que ustedes piensan pues lo disimulan pero muy bien lo disimulan

he leído textualmente documento del ministerio de hacienda del estado español documento del ministerio

no de euskal herria bildu y no es acordar

cuando el señor montoro dijo las comunidades autónomas déficit cero coma tres y ustedes dicen comunidad autónoma del país vasco déficit cero coma tres

jolines jolines es que hay que tener hay que tener lo que hay que tener eso no es un acuerdo eso es decir que vale que estupendo y luego venimos de decir que hay que relajar la senda del déficit que deberíamos poder adaptar el objetivo a nuestra situación económica

y ustedes nos han dicho por aquí cientos de veces les hemos propuesto ir como una voz ir

a defender unas cuestiones a defender que tienen que estar acorde a la realidad económica y social de este país y ustedes nos han hecho tururú y ustedes sabrán por qué yo ya lo sé pero ustedes también o sea que no nos vengan con eso pertsonak helburu y que nosotros

una mujer y sus tres hijos dejan su piso en vitoria piso propiedad de alokabide dieciocho de diciembre del dos mil quince

es del deia esto no lo ha escrito euskal herria bildu pertsonak helburu venga hombre por favor

que las limitaciones el dinero es limitado hay para todo pero no hay para más

que esto es porque ustedes quieren que es voluntario que ustedes

fiscal que ustedes han optado por poner en el punto número uno y se lo he dicho ya varias veces deuda y déficit y después ya las personas un poquito más tarde con lo que nos queda hacemos lo que podemos y que cuando me ha dicho lo de llantos de plañidera

insisto llantos de plañidera no son llantos son llantos de plañidera

porque les pagaban por llorar porque les pagaban por aparecer que alguien tenía pena por aquel que había fallecido y eso es lo que pasa aquí

y nos vienen aquí día sí y día también a decir nos gustaría tener más no se puede hacer más

nosotros también quisiéramos y es porque ustedes así lo quieren porque ustedes han optado por no

rebájennos los impuestos eso sí solo a nosotros a las rentas altas a los curritos y curritas que sigan pagando pero a nosotros rebájennos quiten el impuesto del patrimonio rebajen el impuesto de sociedades bueno ya veremos cuánto tardan porque

en modificar el impuesto de las grandes fortunas bien poquito han tardado ustedes y así una tras otra una tras otra de verdad

lo miren por dónde lo miren este presupuesto no responde

toda la legislatura ustedes han decidido estar

esperando a verlas venir y así está pasando lo que está pasando usted dice que también es incidencia la reducción del desempleo de la actividad de este gobierno

porque no puede ser consecuencia de la actividad de este gobierno cuando las empresas pasan de lanbide

lanbide no existe para los contratadores y contratadoras de este país no les interesa por lo tanto ahí creo que no vamos bien

cuando gente interna del propio gobierno

insisten en que la pobreza a tendido al alza en el ejercicio dos mil quince dos mil quince pobreza al alza los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos no decaen pero ustedes con cuánto hemos dicho con uno millóncito más que el año pasado nos dicen que va a dar para todos mentira no va a dar

eso sí para el campo de fútbol de aquel pueblo unos cuantos millóncitos porque al parecer el futuro de este país está en el fútbol

en todas estas cuestiones que a tanto les han debido importar al partido socialista y a ustedes

también les importan para terminar sinceramente la autocomplacencia insisto

claro que lo sé yo también vengo del sector privado y yo también he trabajo en empresas donde

todos los días a las ocho de la mañana todos los días pero no se hagan trampas al solitario

solo es mirar a la generalidad es mirar al que está mejor y no se puede hacer uno trampas al solitario mirando

como hacen ustedes habitualmente o utilizar maliciosamente porque

los indicadores son objetivos que me lo digan a mí los economistas sabemos que los indicadores no son objetivos

y ustedes miran siempre muy hábilmente la media de la unión europea global por qué

porque ahí está polonia porque ahí están muchísimos países que todos sabemos que su calidad de estado del bienestar dista mucho de ser del que nosotros queremos por lo menos

entonces claro si nos hacemos trampas al solitario siempre vamos a salir por delante salir siempre en la foto delante es maravilloso muy fácil comparándose siempre con quien a uno le interesa pero así no llegamos a ningún sitio y si queremos que este país avance de una vez por todas hay que ser osados

y hay que decidir aquí y no seguir como siguen ustedes

y repartiendo alpiste porque es lo que han hecho con estos presupuestos repartir alpiste a esos señores y a esas señoras para que estén

el uso de la palabra eskerrik asko

haciendo un análisis real como os dijo egibar en el debate de la enmienda a la totalidad

porque solo habéis presentado enmiendas reales por valor de cero coma tres por un cero coma tres por ciento bai urruzuno jauna

pero es que es verdad que podemos utilizar el dinero que procede del tav en la encomienda de gestión eta zuk esan zenuen ez ezin da erabili

en los socialistas vascos hemos decidido por tercer año consecutivo facilitar la aprobación de los presupuestos del país vasco en primer lugar por responsabilidad

que no disponer de ningún presupuesto porque creemos que hacer oposición es algo más que oponerse al gobierno esa es una de sus funciones pero sin dejar de lado

en el rumbo que marca el programa propio buscando el interés general eso es lo que cree y lo que hace el grupo socialista y lo que procura llevar a cabo con la máxima coherencia también en el proceso de elaboración de estos presupuestos recordarán que no nos tembló el pulso hace tres años para forzar la retirada del primer proyecto de presupuestos que presentó este gobierno lo hicimos con la misma coherencia porque con la escusa de la reducción del déficit en aquel presupuesto se daba un tajo en el gasto de más de mil millónes

y falta de recursos para combatir el paro y el estancamiento de la actividad económica y en esa oposición coincidimos con muchos de ustedes en esta cámara pero desde entonces han sucedido algunas cosas el lehendakari y su partido

se agarraron a la oferta generosa que hizo el partido socialista de alcanzar un pacto de país

la reactivación de la economía y el empleo y la modernización de la estructura institucional y se empezó a hacer aquello a lo que el pnv se negó cuando estuvo en la oposición una reforma fiscal que repartiera más justamente las cargas tributarias y que garantizase los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos señalados este año

como bien sabe el gobierno hemos vuelto a facilitar que salgan adelante los presupuestos para el dos mil dieciséis como lo hicimos en los tiempos más turbulentos del lehendakari ibarretxe por coherencia y por responsabilidad porque queremos que la mejora de la recaudación tributaria originada por la reforma fiscal que pusimos en marcha se traduzcan en el afianzamiento de los servicios públicos y en el aumento de la inversión en conocimiento

es cierto que no se hace con la intensidad que nos hubiera gustado entre otras cosas porque esto hubiera requerido pasos previos más decididos en la lucha contra el fraude fiscal y también una fijaciónmás transparente y rigurosa de los ingresos tributarios previstos por las diputaciones forales

en la que nadie conoce las cartas del otro y donde la cantidad va variando mágicamente de un mes al siguiente porque estamos hablando del dinero que aportamos todos los vascos y vascas sin embargo en este presupuesto y gracias en gran medida a alasaportaciones del partido socialista se duplica la partida destinada a paliar la pobreza energética así como la dotación de las aes

los casos de necesidad más urgentes del mismo modo este presupuesto asegura el cumplimiento de dos leyes importantes aprobadas por este parlamento en primer lugar la cobertura del derecho subjetivo a una vivienda digna para quienes no puedan pagársela por sus medios y también que no se dedique ni un euro público a explorar o explotar recursos gasísticos mediante el fracking en el territorio de la comunidad autónoma y también fuera de ella

como bien sabe la consejera de desarrollo económico y mal que le pese siento decirlo a la señora

a la incentivación del empleo y la formación con programas específicos de parados de larga duración y jóvenes

entre otros fines unas medidas que se complementan con las enmiendas parciales del partido socialista y que como he señalado además de reforzar las aes y las ayudas contra la pobreza energética

aportan más recursos para tratar a los enfermos de hepatitis cien y oncológicos

medio millón de euros a impulsar zonas desfavorecidas de álava por todas estas razones los socialistas vascos hemos querido y hemos conseguido que euskadi